muchas gracias presidenta en principio me voy a dirigir al señor urkullu que es a quien le hemos hecho

miembro del gobierno en todo caso los argumentos son los mismos efectivamente seguimos hablando del modelo institucional vasco algo hemos comentado

en una pregunta relacionada con la posibilidad de reformar las leyes electorales vascas para alcanzar una igualdad de voto real cosa que a día de hoy no se da he incluido el asunto de la fiscalidad en el punto anterior como consecuencia de que algún miembro

de su gobierno había planteado la posibilidad de reformar la ley electoral

este parlamento asuma las competencias fiscales en todo caso me centro lógicamente ahora en el asunto de la interpelación

para nosotros evidente de que este parlamento no decida solamente sobre los gastos sino que decida también sobre los ingresos es decir

para nosotros absolutamente indispensable de que en este parlamento se debata pero no solo se debata sino que también se acuerde la fiscalidad para el conjunto de euskadi la fiscalidad que afectará a los ciudadanos vascos independientemente del territorio histórico donde resida nosotros lo venimos desde nuestra propia fundación como partido político creo que no engañamos a nadie somos perfectamente coherentes el disparatado modelo institucional y fiscal vasco condiciona no solamente las políticas fiscales

sino en general toda la política y todas las decisiones políticas del país vasco en nuestra opinión y en opinión de muchos

autónoma como euskadi de dos millónes de habitantes tenga cuatro parlamentos y tres haciendas forales al margen del control

de sentido que existan en euskadi tres políticas fiscales diferentes y que los ciudadanos vascos paguemos distintos impuestos en función del territorio histórico donde residamos esto no lo entiende nadie o cada vez lo entiende

euskadi es la única región con amplias competencias fiscales de la ocde

en su parlamento lo hace formalmente a través de tres votaciones en cada una de las tres juntas provinciales podría hacerlo a través de la aplicación de la ley vasca tres barra mil novecientos ochenta y nueve en la que se especifica que el parlamento vasco tiene competencias fiscales y puede fijar

no se ha hecho en todo caso y en nuestra opinión lo más conveniente es que las competencias fiscales sean trasladadas de las juntas generales de los territorios históricos

como paso previo para alcanzar no lo negamos sino que también lo décimos permanentemente por activa y por pasiva no solo una política fiscal en el conjunto de españa

los gastos pero no podamos decidir sobre los ingresos este sistema no solo rompe la igualdad

nos impide ahí están los datos alcanzar la mejor política fiscal posible este hecho provoca además desarmonización fiscal es decir

desarmonización más allá de las decisiones que se tomen en las juntas generales de los territorios históricos más allá del color político

lo cierto es que es este sistema el que facilita la desarmonización y por lo tanto la desigualdad entre ciudadanos

y coordinar las políticas fiscales tenemos el órgano de coordinación tributaria cuyo modo de funcionamiento es

absolutamente opaco y nosotros defendemos claridad y transparencia nos parece indispensable que cuanto antes

a este parlamento euskadi precisa de un sistema tributario armonizado y estamos abiertos a que junto a ello podamos debatir del modelo foral en su totalidad permanentemente creo que planteamos este debate incluida la ley electoral

electorales sin miedo creo que no hay que tener miedo a modernizarnos creo que no hay que tener miedo a cambiar las cosas creo que no hay que tener miedo a plantear todas las modificaciones legales que sean necesarias para garantizar

y más igualdad por lo tanto nosotros somos partidarios de modificar radicalmente este sistema y con él el entramado institucional vasco y las leyes que sean necesarias para alcanzar este objetivo constitución española

ley de territorios históricos las leyes que fueran necesarias

ningún tipo de miedo no podemos vivir permanentemente anclados en el pasado efectivamente seguramente me digan como en otras ocasiones

pero el consenso lógicamente depende también de los partidos políticos especialmente de los partidos políticos mayoritarios

realizarlos y que no pasa nada no es que no pase nada sino que serían cambios legales que vendrían bien para el conjunto de los ciudadanos por eso señor lehendakari

para que nos responda sobre los propósitos del gobierno vasco para que en el parlamento vasco se debata y se acuerde la política fiscal y poder alcanzar de este modo

armonizado y una sola política fiscal muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna jarraian jaurlaritzaren ordezkaria den gatzagaetxebarria jaunak dauka hitza

señor maneiro sobre esta cuestión hemos tenido oportunidad de debatir algunas veces en la anterior legislatura usted y yo

de mi partido usted parte de una concepción política

que dentro de las discrepancias políticas que tiene upyd con nuestro partido político

que hay que modificar radicalmente el sistema institucional vasco y que le parece disparatado

diferentes procesos electorales creo que son dos el anterior y este y usted expone su proyecto político

como obviamente tiene que ser y con toda legitimidad y su partido político tiene el respaldo en las urnas que tiene y

su formación en el parlamento nosotros también vamos a las elecciones con un proyecto político con una oferta electoral y tenemos el respaldo que tenemos pero dicho eso el debate de las ideas el debate de los contenidos del sistema institucional es oportuno y usted lo ha traído a la cámara nuevamente y yo voy a debatir con usted no coincido como dice en su interpelación que es un modelo institucional

fiscal es una consecuencia del régimen institucional

la comunidad autónoma de euskadi para usted eso es un disparate

y es que los territorios de araba bizkaia y gipuzkoa conforman la comunidad autónoma y otros territorios que conforman también el pueblo vasco y que no están en la comunidad autónoma como pueden ser navarra

pero en lo que es la comunidad autónoma una pequeña corrección señor maneiro

representativos de la voluntad democrática de los territorios son las juntas generales que se habla de juntas provinciales simplemente hacerle

la discrepancia sobre esa cuestión sobre el sistema institucional tampoco

no coincidimos con el planteamiento que usted hace también sí que le quería hacer una pequeña corrección

la representación de los vascos por territorios en esta cámara

y es el estatuto el que dice que la representación de los vascos por cada territorio

en esta cámara tanto cambiando la ley electoral no hacemos nada la ley electoral es una ley material de fondo que establece el modelo electoral

pero la fijación del marco de la representación de los vascos por territorios en este parlamento como institución no está establecido en la ley electoral sino en el estatuto se lo digo porque

de carácter sustantivo pero no una modificación en cuanto al carácter y al alcance de la representación de los vascos por territorios

modificar el sistema institucional más profundamente usted aboga por modificar la constitución

es un comentario que se lo hago con toda consideración que está también la ley del concierto económico que es muy importante porque la ley del concierto económico atribuye competencias a las diputaciones forales y a las juntas generales y se trata también de una ley pactada

de una gran trascendencia pero es una ley estatal al igual que el estatuto de autonomía que en este caso también es ley estatal pero

de ley orgánica usted es partidario de una reforma profunda y ya se lo ha dicho el lehendakari en la primera intervención que ha tenido en el debate con usted estos temas

cuando hablemos del marco jurídico político nuestro que usted pretende modificar

entonces este debate sobre el autogobierno y el marco jurídico político

si sus señorías entienden que se tiene que producir porque son soberanos para decir lo que la cámara puede debatir o no debatir

a la consideración de lo que ustedes estimen oportuno al respecto pero

que se constituya un foro para el análisis del autogobierno y la modificación del marco

otros también tendremos nuestras propuestas y todos los grupos creo que vendrían con sus propuestas por lo tanto

pero mantener también la discrepancia o la diferencia de opiniones con su grupo parlamentario y ahora voy a entrar en la segunda parte de su exposición

el debate general en ese ámbito habla usted de la fiscalidad la fiscalidad es un brazo una vertiente de este marco institucional qué dice el marco institucional que el competente para establecer mantener y regular

son los territorios no obstante las instituciones comunes en este caso representadas por el parlamento del gobierno facultades de colaboración coordinación y armonización en la política tributaria vasca así está también establecido y desarrollado en un texto como es la ley de territorios históricos que desarrolla el estatuto de autonomía en esa materia y luego también la ley de armonización fiscal

lo que usted plantea yo quiero hacerle

y es el traslado de las facultades normativas ex novo al parlamento

estatuto concierto ley de territorios en ese foro las facultades del parlamento en esta materia no son sustituir a la diputación foral de gipuzkoa

porque el marco que tenemos es el que establece que la facultad reguladora al respecto es de esas instituciones no podemos regular ex novo

sin tener que respetar las competencias de otras instituciones porque señor maneiro

y las tiene que ejercer aquel poder público que de conformidad con el bloque del sistema de reparto competencial es el competente y entro ya en la tercera fase de su exposición

en lo relativo al papel de una institución común como puede ser esta cámara en cuanto a la armonización o desarmonización esa facultad está ahí está prevista

en el estatuto está prevista en la ley de territorios históricos está prevista en la ley de mil novecientos ochenta y nueve pero le quiero hacer una acotación la armonización

cuando esta cámara ha desarrollado la previsión del estatuto sobre armonización esta cámara en la ley de mil novecientos ochenta y nueve dice que puede haber

de normas con contenido distinto y cuando se estime por la cámara que procede la armonización hacerla hasta ahora

que había una desarmonización ninguna vez

o a las de álava porque la competencia es de ellas esta cámara puede entender

fase de la explicación que yo quiero darle a su interpelación y es

cuándo existe desarmonización desarmonización es un concepto ya

desarrollado y profundizado en diferente jurisprudencia tributaria en la materia y la desarmonización no se mide en relación a un sujeto pasivo a un hecho imponible de un tributo o un tributo con un tributo en concreto la desarmonización o la armonización

a la presión fiscal global equivalente del conjunto del sistema es decir puede haber diferencias normativas

por esta cámara que hay desarmonización porque la desarmonización se produce cuando la presión fiscal global equivalente del conjunto del sistema de un tributo o de un elemento de un tributo de un territorio a otro tiene diferente tratamiento normativo y eso es así señor maneiro está normado así y creo que los grupos de la cámara lo conocen nunca ningún grupo parlamentario por encima de unas juntas generales ha venido con un texto normativo por una ley concreta para armonizar y

una regulación tributaria distinta y ha habido muchos eskerrik asko

muchas gracias señor gatzagaetxebarria efectivamente ha empezado usted

suyo creo que al menos en cuatro o en cinco ocasiones durante los últimos cuatro años me ha recordado que ustedes tienen veintisiete escaños

dénos unos cuantos años más que al fin y a cabo tenemos únicamente cinco años en todo caso

el debate de las ideas que es el que nos interesa no el debate de cuantas personas les votan a ustedes en estos momentos

votan a upyd yo creo que el asunto son las ideas

aquello de esto es así tan habitual en los partidos conservadores en los partidos foralistas en los partidos que no quieren cambiar nada como en los últimos tiempos estamos

representantes institucionales esto es así sí ya lo sé señor gatzagaetxebarria que esto es así por un lado al principio parecía usted un universitario intentando explicar cual es el modelo foral que padecemos cual es el sistema que tenemos y cuales son las leyes actualmente

perfectamente el tema es que nosotros queremos cambiar esta realidad sin ningún tipo de miedo y hay otros representantes políticos y otros partidos políticos que quieren que todo siga igual básicamente el debate es ese

argumentos de fondo como para demostrar que este sistema el sistema foral o el sistema fiscal nos beneficia en algo y si tiene algún tipo de sentido esa es la realidad yo creo que tenemos en euskadi un problema cierto que es el foralismo obtuso

a los derechos y al bienestar de los ciudadanos pero no hay ningún tipo de argumento razonado o razonable para mantener este sistema que además por otro lado choca con la idea

que nos ayude a salir de la crisis vamos a europa y efectivamente enseguida décimos que el futuro tiene que ser una sola política fiscal pero en euskadi tenemos tres distintas efectivamente por parte de usted por parte de otros partidos políticos de diferentes representantes institucionales se nos dice que este es nuestro modelo

que es nuestra historia que forma parte de nuestra historia que forma parte de nuestra identidad que está en la constitución que habría que cambiar la constitución que habría que cambiar el estatuto de gernika que habría que cambiar el concierto económico no tenemos nosotros ningún problema

e impulsar las reformas legales que sean necesarias para modernizarnos y para garantizar no la uniformidad absoluta sino al menos un mínimo

que por ejemplo como consecuencia de este sistema treinta años después no

un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal a nosotros esto nos parece ciertamente un disparate o que los ciudadanos vascos paguen distintos tributos en función del territorio histórico donde residan o que estén en vigor distintos impuestos sobre el patrimonio

pueda estar en vigor solamente en algunos de esos territorios históricos a nosotros esto nos parece

problema ningún problema que hay que cambiar la ley de concierto económico se cambia la constitución lo que sea necesario para modernizarnos creo que hay que plantear algún tipo de argumento más que decir que el modelo es así que siempre ha sido así y decir

argumentos de fondo ya digo en nuestro caso no pretendemos queremos modernizarnos y garantizar la mayor igualdad posible lo cierto es que en el último debate monográfico nosotros presentamos una propuesta de resolución que planteaba que este parlamento asuma la competencia legislativa en materia fiscal y que

residida en las juntas generales de los territorios históricos efectivamente esa propuesta de resolución no salió pero en todo caso nuestra idea es seguir planteando este asunto y que finalmente

insisto para garantizar la mejor política fiscal posible para garantizar más igualdad y más bienestar para los ciudadanos que es realmente lo importante gracias

nosotros también empezamos hace más de cien años como proyecto político y empezamos humildemente como usted

las mayores venturas no en lo político porque no me gustaría que su proyecto político tuviera

el éxito que nuestro proyecto político tuvo cuando hace más de cien años empezó a crecer en este país pero bueno eso se lo digo con toda consideración pero creo que es importante reflejar que usted tiene un proyecto

y presentado legítimamente y tiene un apoyo en este país

posiciones cambien pero felizmente para nosotros hemos sido en las últimas elecciones también el partido político

en el conjunto de la comunidad autónoma mire

con la vinculación con el criterio de presión fiscal global equivalente nadie ha entendido en treinta años que existe desarmonización porque la desarmonización existe cuando sobre elementos estructurales de un tributo se entienda

y en varios ejercicios económicos existe una presión fiscal distinta porque el parámetro de medida es la presión fiscal global equivalente del conjunto es así en la armonización adentra entre territorios y armonización con el estado porque la armonización juega en los dos

yo le tengo que hacer también una reflexión complementaria usted dice diferencias de territorios no todos los vascos de andoain o los de markina o los de

porque existe un principio que es el de la autonomía tributaria cada municipio tiene una autonomía para regular determinadas tasas

tiene que entender que eso es así y es más mire le voy a hacer otra reflexión el sistema tributario del estado con las diferentes modificaciones que ha habido en los últimos quince años concesión de tributos directos

sin capacidad normativa permite que la posición de un ciudadano español ante el poder tributario de cada departamento de hacienda de cada comunidad autónoma sea distinta es distinto en andalucía o en extremadura que en madrid

que está en contra del sistema tributario actualmente vigente igual está

pero se lo digo porque en españa se funciona así y le pongo un ejemplo de cómo

en cada comunidad autónoma o en cada municipio con los ejemplos que le he puesto es distinto porque existe una autonomía tributaria

que han sido objeto de cesión tributaria en unos casos de meramente gestión y en otros casos con capacidad normativa

a que las diferencias normativas existen y no se ha entendido

ni ad intra ni ad extra y cómo se entiende la armonización

en esa materia respecto a lo que usted dice de la fiscalidad en el parlamento ya sé

que usted tiene un proyecto político en virtud del cual quiere que las juntas generales y diputaciones no tengan competencias tributarias pasen al parlamento pero es algo temporal

la discrepancia al respecto tanto el paso de la competencia normativa plena no de armonización es una modificación que usted la planteará

del debate del marco del autogobierno pero ya anuncia usted que lo que es de carácter temporal porque quiere que esté residenciada en las cortes en cuanto

interpelación debatir todo en este parlamento porque este parlamento tiene plena legitimidad para debatir

yo le tengo que pedir un respeto a una cuestión y es al principio de competencia

de la consideración o de la oportunidad política del momento en este momento el marco atribuye la competencia normativa a las tres juntas generales gipuzkoa álava y bizkaia

porque creo que un órgano institucional como el órgano de coordinación eskerrik asko

muchas gracias señora presidenta buenos días señoras y señores parlamentarios señor lehendakari miembros del gobierno

contenciosa es una pregunta desde la preocupación a mí no me gusta hablar del tema que voy a hablar no no me gustaría

con álava y con su situación y realidad política e institucional pues generalmente siempre se hace para mal

y para distorsionar y es necesario más sosiego más calma por parte de algunos responsables políticos no generar debates

en la representatividad de los territorios históricos en el parlamento vasco esta vez el diputado general de bizkaia en una conferencia ofrecida la semana pasada

al unir dos cuestiones que ni son factibles hoy por hoy ni contribuyen a generar sosiego político paridad y sistema fiscal fueron expresiones utilizadas y conectadas para algún fin que no alcanzamos a conocer si no es el de generar un debate improcedente desde su puesto institucional

parece poco prudente incidir en planteamientos estériles y mezclar sobre todo imposibles desde un punto de vista político no aporta nada para nuestro grupo

de cómo valora el lehendakari si valora como adecuadas y oportunas las manifestaciones realizadas por el diputado general de bizkaia a referirse en la citada conferencia al cambio de modelo institucional muchas gracias

formulada por el señor maneiro representante del grupo mixto upyd ya

y además le digo que como lehendakari ni valoro como adecuadas ni inadecuadas ni valoro como oportunas ni como inoportunas las manifestaciones

gracias señora presidenta señor lehendakari esa tercera persona es

institucional en la que nos movemos pues sus palabras son importantes y además

establece líneas que los demás recogemos y entendemos y que nos preocupa y además señor

pedir realismo a la oposición de acuerdo y nosotros

vamos a funcionar hemos funcionado y seguiremos funcionando en el partido popular pero tiene que exigir usted también realismo a sus compañeros de partido sobre todo que dependen de alguna manera de una determinada coordinación institucional y hacerlo de esa manera y por eso le pedimos

y que valore si son oportunas y adecuadas esas manifestaciones

generar vuelvo a decir debates imposibles antiforales algún grupo político desde nuestro punto de vista es decir para debatir el señor diputado regional de bizkaia lo que quería era debatir con el partido socialista de euskadi una cuestión y lo ha hecho

entendiendo y metiéndose en un debate que desde luego no era procedente desde nuestro punto de vista usted en su discurso de investidura habló de muchas

fortalecer el autogobierno el modelo institucional vasco se ha demostrado eficaz durante las últimas tres décadas considero que la mejor manera es reforzarlo es proceder a su actualización es decir la actualización va a ser las claves en las que

cuestionar nuestro sistema de paridad mezclarlo con otros temas a nosotros sí nos preocupa y nosotros creemos que tiene que quedar muy clara esa cuestión usted se refirió

nuestro sistema institucional ha funcionado bien pero estamos en un momento de crisis y nosotros estamos

álava no tiene que ser la pagana de debates políticos en esta cuestión y por eso mismo pedimos señor lehendakari que se moje un poco más en relación con las palabras del eskerrik asko

bi gai desberdin lotu señor carmelo barrio insisto en la respuesta

este modelo es una aportación realizada por el partido nacionalista vasco señor barrio creo en él desde su concepción

demostrado que funciona reconozco también como lo he dicho estar abierto a su adecuación y a su actualización si ese fuera el debate en esta cámara

tenemos por un lado una propuesta para la reforma del sistema fiscal de la que hemos hablado en intervenciones anteriores y tenemos por otro lado una propuesta para revisar

no sé si con subterfugios la arquitectura institucional son dos temas distintos

son dos temas que este gobierno está dispuesto a analizar y a acordar lo hemos dicho públicamente lo reiteramos lo reitero señor barrio critica usted en su formulación que se conecten dos cuestiones con el fin de generar un debate improcedente y así se ha manifestado usted también

le invito yo a que desconecte los dos temas tal y como se refleja en la intervención del señor bilbao al que usted alude la reforma del sistema fiscal es un tema importante

una propuesta de reforma planteada por el partido nacionalista vasco espero y deseo que seamos capaces de llegar además a un acuerdo la situación económica y presupuestaria que hoy vivimos creo que no lo está demandando

que es la que usted menciona es la paridad en la representación institucional de esta cámara me he manifestado anteriormente en respuesta al señor maneiro se ha manifestado también el señor gatzagaetxebarria consejero de hacienda y finanzas de dónde deriva

le reitero que creo firmemente en el actual modelo y le recuerdo que la propuesta de representación territorial insisto fue realizada por el partido nacionalista vasco señor barrio

y se ha demostrado eficaz también entiendo reitero que todo es mejorable y por ello es por lo que reitero también en la respuesta anterior

que he propuesta que en esta cámara sea la conveniencia de analizar si se quiere

y el futuro del autogobierno vasco porque el futuro evidentemente está abierto y solo pido que respetemos tres principios una visión integral y completa un máximo grado de consenso y garantizar el mismo grado de cohesión social y territorial que hemos logrado con el actual modelo y que como decía antes también no sé si en todos los territorios en cada uno de los territorios esto está siendo así en cuanto a grado de cohesión territorial

muchas gracias presidenta en lo últimos

en los últimos tres presupuestos lo cierto es que el partido socialista de euskadi y el partido popular han destinado nada más y nada menos

euros al año a financiar a las ikastolas francesas

de los impuestos de todos los vascos a financiar las ikastolas francesas es decir han destinado nuestros impuestos

reglada de un país extranjero es decir no es dinero destinado a fomentar el uso del euskera sino que es dinero destinado a financiar reglada de un país extranjero esta es la realidad de los hechos por mucho que alguna parlamentaria suspire en estos momentos es cierto que esto también lo hicieron antes

y es cierto que el partido socialista de euskadi y el partido popular dijeron que nunca más volvería a ocurrir sin embargo ocurrió y en los últimos tres ejercicios

lo cierto es que el partido socialista de euskadi y el partido popular han destinado de nuestros impuestos cuatrocientos cincuenta mil euros al año a financiar la educación reglada extranjero es curioso porque el partido socialista de gipuzkoa y el partido popular de gipuzkoa se quejaron amargamente y alzaron la voz cuando la diputación foral de gipuzkoa destinó una partida presupuestaria a financiar las ikastolas navarras debe ser que están poco

de gipuzkoa de estos dos partidos políticos porque ellos han venido haciendo lo mismo

últimos ejercicios insisto a financiar la educación reglada de un país extranjero no a impulsar el fomento del euskera

reglada de un país extranjero la pregunta por lo tanto es que si esta financiación de la educación reglada de un país extranjero la va a mantener el actual gobierno el actual gobierno del partido nacionalista vasco o va a seguir haciendo lo que el partido popular y el partido socialista de euskadi han venido haciendo durante los últimos tres ejercicios por mucho que alguna parlamentaria sonría cuando yo le planteo esta pregunta gracias

hoy lo reitero que este gobierno siempre respetando las leyes que imperan allí donde pretendemos actuar tiene intención de mantener y de impulsar el acuerdo económico suscrito

organismo público del euskera que como usted sabe engloba además de a este gobierno a diferentes departamentos del gobierno francés

y al consejo de aquitania ese es nuestro compromiso eskerrik asko eskerrik asko uriarte andrea maneiro jauna zurea da hitza

al parecer ustedes van hacer lo mismo que hicieron en los últimos tres años

que es financiar la educación reglada de un país extranjero lo cierto es que en francia ya existe una entidad pública encargada de fomentar el uso del euskera y tiene un presupuesto anual de tres millónes de euros aproximadamente dejemos por lo tanto que los ciudadanos franceses decidan qué hacer con su dinero preocupémonos nosotros los vascos de con nuestros impuestos

la mejor educación posible mantener la mejor sanidad posible y mantener el mejor estado del bienestar posible a nosotros nos parece ciertamente contradictorio que se nos anuncien recortes sociales y sin embargo este gobierno

a destinar dinero a iniciativas que nosotros planteamos que en este momento no son absolutamente indispensables no son prioritarias y por lo tanto le animamos a que no haga lo que en los últimos años ha venido haciendo

de nuestra historia esta es nuestra posición política y volveremos a traer este debate

usted afirma en su pregunta que el gobierno vasco a destinado uno coma treinta y cinco millónes de euros a la federación de ikastolas del país vasco francés y acaba afirmando que no le parece razonable que el gobierno vasco siga aportando dinero para la enseñanza reglada en un país extranjero

que iparralde debe ser para nosotros un país extranjero a todos los efectos incluso en cuanto

independientemente de cualquier otra connotación política que afecte directamente al ministerio de asuntos exteriores el país vasco francés o iparralde es decir lapurdi behe nafarroa y zuberoa forman parte del conjunto del país vasco

tierra del euskara que es incluso reconocida por enciclopedias británicas nada sospechosas de militar en el nacionalismo vasco

de europa y del mundo no hable usted de tierras vascas extranjeras

tal y como usted ha dicho a lo largo de los tres últimos años el gobierno vasco

ha destinado uno coma treinta y cinco millónes a seaska usted sabrá lo que afirma en cualquier caso me alegro profundamente de que el anterior gobierno tuviera reconocida

incluso por encima de delimitaciones fronterizas estatales pasaden astean azaldu genizuen iparraldeko ikastolak

gracias señora presidenta buenos días a todos de nuevo hablando de justicia gratuita en esta cámara

como algún otro parlamentario en esta cámara sino porque

que provocó el controvertido decreto ciento diez barra dos mil doce no acaba de llegar dos meses lleva como consejero señor erkoreka y

lugar a muchas dudas sobre la actuación de su departamento en lo que se refiere al cumplimiento de los compromisos

la confianza de este parlamento y de este grupo en su actuación y digo en cierta medida porque la situación ha cambiado algo desde el momento

en este momento voy a comenzar

señalando que el derecho al acceso a la justicia para los que no tienen ingresos reconocido

pero también con una regulación adecuada porque de otra forma sin recursos

y el propio sistema judicial y en este momento no se cuenta con una regulación adecuada el pasado uno de septiembre entró en vigor el nuevo decreto

que vino a desmontar un servicio que funcionaba bien

y que había dado lugar a pocas quejas supongo que compartirá conmigo que esto es así porque si bien es cierto que usted no estaba el grupo que sustenta su gobierno estaba presente y así lo expresó también en esta cámara en numerosas ocasiones por contra el nuevo decreto lejos de mejorar ha provocado unas disfunciones que ya se venían denunciando

y de los colegios de abogados y ha quedado más que

después de la entrada en vigor del mismo ahora ya no son denuncias es una realidad constatable el empeoramiento del servicio con la nueva regulación a pesar de la falta de modificación de la normativa se dijo que si se hacía finalmente esa modificación

con aquellos que gestionan el servicio y que lo prestan con los colegios de abogados cosa que no sucedió y sus aportaciones y sus sugerencias

como he dicho aquí en varias ocasiones y ahora quiero reiterarle a usted señor consejero los colegios de abogados en la negociación del decreto velaron

y no únicamente por defender sus intereses profesionales como se les acusó desde la más absoluta demagogia por parte de responsables máximos del anterior departamento

y fue teniendo en cuenta ese derecho a la justicia gratuita la razón por la que los colegios de abogados mostraron sus discrepancias con ese decreto desde el principio discrepancias formales

y lo mismo hicimos los grupos en esta cámara cuando presentamos numerosas iniciativas para que el decreto no entrara en vigor por parte de los profesionales a este nuevo gobierno se les planteó desde el principio una serie de cuestiones que van más allá de los casos fallidos por mucho que usted señor erkoreka

se haya centrado únicamente en este tema en la comparecencia del día veinte y así se lo hicimos saber también desde este grupo yo no sé la razón espero que la misma

hacer ver que aquí solo se defienden unos intereses económicos que solo se defienden unos honorarios cuando ello no es así señor erkoreka

posesión pero a principios de enero le hicieron llegar una serie de planteamientos y es dentro de esos planteamientos la primera cuestión

era la de necesidad de simplificación de los trámites porque la exposición de motivos del ecreto no dice la verdad al señalar que la regulación clarifica las funciones

no solo para el justiciable si no para los propios abogados porque algunos se encuentran regulados de forma ininteligible

hace muy poco para garantizan el acceso a la justicia gratuita

unido al aumento del volumen de los mismos hace que se encuentre en este momento absolutamente atascado tanto el servicio de orientación jurídica

como la comisión de justicia gratuita que tiene más de mil casos por resolver por lo tanto una de las primeras cuestiones a resolver y por la que nosotros le preguntamos en esta cámara

y esos retrasos podían haberse evitado de no haber entrado en vigor actual regulación pero bueno como ya la tenemos ver cómo se va a solucionar además de cómo se va a liberar a los letrados de llevar a cabo los trámites

de actuar más como administrativos que abogados de estar más pendientes de un expediente administrativo que de la dirección del asunto además también queremos saber

si por parte del gobierno vasco se va a sufragar el coste íntegro del servicio de justicia gratuita porque la organización de este servicio es cierto que corresponde o que está delegada mejor dicho a los colegios de abogados pero es un servicio público

los que no lo están están sufragando buena parte de la organización de este servicio por parte del gobierno vasco no se está abonando la integridad del mismo en estos momentos colegios como el de bizkaia han aumentado con cargo a sus fondos el personal destinado a la organización del servicio

público por mucho que este delegado a los colegios de abogados o no vaya desde aquí nuestro grupo señor erkoreka comparte con usted igual que con otros grupos de esta cámara como no podía ser de otra manera que el beneficio de justicia gratuita

solo a aquellos que carecen de recursos suficientes

debe velarse por que se utilicen correctamente y porque como le digo solo aquellos que acrediten insuficiencia de recursos puedan ser beneficiarios de este servicio

de lo que haga su defendido en la tramitación del beneficio de justicia gratuita

de si falsean datos o no los falsean no se puede garantizar el derecho de justicia gratuita a costa de no pagar a los profesionales si finalmente no tienen derecho a esa justicia gratuita desde luego que la administración debe reclamarle con todos los medios a su alcance pero como le digo lo que no puede ser es que la final los letrados no vean su labor remunerada

para este tipo de supuestos fondo cofinanciado con fondos públicos

mire señor erkoreka yo no sé si los colegios estarán de acuerdo

con muchos compañeros y no están de acuerdo en absoluto con este fondo pero bueno nosotros

saber y lo que le planteamos en esta interpelación es cómo se va a regular ese fondo y cómo se va a solucionar esta cuestión también existen otras cuestiones que le plantearon como la ecuación de los módulos de compensación o la adecuación de los letrados de guardia por resolver asimismo como usted dijo en la comparecencia existe un borrador de proyecto de ley de justicia gratuita a la que luego el decreto se tendrá que adaptar y nos gustaría saber si van a tener en cuenta las opiniones de los profesionales en la redacción de ese nuevo decreto y si la van a tener en cuenta

el pnv en la anterior legislatura estuvo en total sintonía con las peticiones de los profesionales y así en esta cámara coincidió con este grupo en muchas ocasiones con estas peticiones los letrados confiaron en que usted iba a cambiar esta situación y en parte por eso

suspendieron las medidas de protesta que tenían anunciadas sin embargo se han visto decepcionados y hasta esta misma semana qué casualidad este martes no han recibido una carta con un mínimo de compromiso por parte del gobierno será que como ha nevado mucho en vitoria por eso la carta ha tardado

cómo se van a solucionar los problemas planteados para garantizar el acceso a la justicia gratuita cuál va a ser el cronograma de reuniones y contactos con los colegios profesionales
y qué medidas se van a tomar para solventar todas las disfunciones que ha provocado el decreto nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea

eskerrik asko legebiltzarburu andrea efectivamente señora llanos como usted

el treinta y uno de enero pasado la cámara aprobó una resolución en la que se instaba al gobierno a adoptar medidas para solventar

generadas por el decreto ciento diez barra dos mil doce y corregirlas mediante una actuación conjunta con los

adelanté en mi comparecencia en comisión la semana pasada básicamente

generales del planteamiento con el que iba a abordar esta cuestión

la semana pasada antes de que registrara la interpelación le expresé mi disposición a explicarle exactamente con más detalle todo lo que abrigaba al respecto luego el lunes me encontré con la interpelación

libremente el derecho a la representación pública que le han encomendado los ciudadanos yo no tengo ningún inconveniente en volver a tratar esta cuestión tantas veces cuantas

en este formato o en otro formato por supuesto en cualquier caso lo que sí quería adelantarle es que la reacción de este departamento nada tiene que ver con el registro de su iniciativa entiendo que usted quiera ponerse la medalla

pero yo ya le adelanté mi disposición a explicarle a usted cuál era mi plan y para entonces estábamos ya en contacto con los colegios de abogados que es

desde el primer día en el que yo tomé posesión como consejero de administración pública

a pronunciamientos que esta cámara llevó a cabo en la pasada legislatura yo no creo necesario irse tan atrás porque sin perjuicio de que a veces suele resultar ilustrativo hacerlo efectivamente casi siempre suele resultar lo cierto que en este caso usted y su grupo parlamentario

que este humilde consejero de lo que el gobierno anterior hizo bien incluso de lo que hizo mal porque fueron su valedor incondicional durante prácticamente toda la legislatura

su proposición no de ley original la que desembocó en la resolución que finalmente aprobó la cámara el treinta y uno de enero hablaba de derogar el decreto vigente y después negociar

con los colegios de abogados de manera que resolviera las disfunciones generadas por el actual no seré yo quien niegue las disfunciones generadas por el actual

fundamentalmente por los colegios profesionales que operan en este terreno

en la comisión es que la derogaciónde ese decreto poco iba a resolver de cara a solventar esas disfuncionalidades de las que habla la resolución porque

la aplicación de la ley del noventa y seis que usted ya calificaba en junio del año pasado de desfasada ahora genera muchos más problemas y es más desfasada que entonces todavía y en el marco de esa

caben diferentes opciones de actuación administrativa a la hora de atender al sistema de justicia gratuita

en las diferentes comunidades autónomas y el hecho mismo de que en esta misma comunidad autónoma haya ha habido dos soluciones diferentes la anterior al decreto ciento diez barra dos mil doce y la posterior la que ha generado y ambas en principio mientras no se declare lo contrario

como cualquier otra que pueda estar en vigor en otra comunidad autónoma siempre y cuando no se haya podido

su nulidad por tanto la mera derogación de ese decreto no resolvía ningún problema

de actuar materialmente operar materialmente

intentar identificar cuáles eran exactamente los problemas las disfunciones generadas por el decreto

sea modificando el decreto o sea no modificando el decreto porque es que la derogación del decreto que usted planteaba se produce

ante la perspectiva de la próxima aprobación en madrid

una nueva ley reguladora de la justicia gratuita que está en fase de borrador y esta misma semana ha sido dictaminada por el consejo general del poder judicial

en el boletín oficial entrando en vigor y desplegando plenos efectos por cierto algunas de las reflexiones y de las exigencias que ha planteado usted en la tribuna hoy en relación con el funcionamiento de la justicia gratuita no está en absoluta recogido en ese borrador de ley que está ya

los transmitiera también a los responsables del ministerio para que fueran acomodando sus previsiones y reformulando el borrador en cualquier caso

el anteproyecto de ley está ya avanzando y en este momento se plantea la modificación como usted decía del decreto actual del decreto en vigor claro el problema es que con esta derogación no resolvemos ningún problema y lo que mientras tanto nos hace el gobierno central es

ahora sí que el decreto del año dos mil doce del gobierno vasco es ilegal ahora sí que es manifiestamente ilegal porque el viernes pasado sorpresivamente sin previo aviso sin consultarlo con las comunidades autónomas competentes en la materia

pero se descolgó con un real decreto ley que altera

establecidos en la legislación de mil novecientos noventa y seis para acceder a la justicia gratuita

que el decreto ahora sí es ilegal y ahora sí hay que readaptarlo hay que modificarlo para adaptarlo a las previsiones de este real decreto ley y por supuesto para lo que nos decía la resolución

hace ya tiempo que estamos pero estamos reuniéndonos con los colegios de abogados a efectos de identificar en primer lugar conjuntamente con ellos como no puede ser de otra manera cuáles son los problemas que plantea

los desajustes que puedan existir cuáles son exactamente esos problemas si los anexos son excesivos o no si las previsiones de los anexos o incluso los trámites burocráticos que se contemplan en el decreto

se pueden simplificar en todo ello estamos conjuntamente con los colegios de abogados por eso

se habían movilizado a este respecto usted habla en plural de los colegios de abogados que están en movilizaciones generalizadas no el que había expresado

no álava o el de gipuzkoa no eran en plural el de bizkaia que es el más importante en número de esto es innegable y con conversaciones con ellos hemos conseguido paralizar las movilizaciones y entablar como era nuestra voluntad desde el principio un diálogo

a identificar exactamente cuáles son las disfuncionalidades de las que hablaba la resolución a efectos de en la medida que sea posible corregirla pero aquí hay un marco que no podemos

de la constitución de la tutela judicial efectiva hay un derecho constitucional pero no

en juego también una exigencia inexorable de los ciudadanos para que actuemos correctamente escrupulosamente en la gestión de los recursos públicos y esto significa como bien nos lo ha puesto en manifiesto los informes que algún día si quiere los comentamos conjuntamente pero los informes emitido por

internos del gobierno vasco encargados de examinar y de dictaminar sobre la adecuación al ordenamiento jurídico de las iniciativas normativas del gobierno

no hay que confundir los fallidos que al final ya sé que los fallidos no son el único problema

por tanto esos dictámenes internos del gobierno vasco ponen claramente de manifiesto que las cantidades consignadas en el presupuesto para financiar la justicia gratuita no pueden servir para cubrir fallidos porque son conceptos completamente distintos y por tanto hay que habitar formulas diferentes a usted no le gustará o a algún abogado es posible que no le guste la fórmula que hemos propuesto estoy dispuesto a escuchar cualquier otra alternativa siempre y cuando

de las consignaciones presupuestarias destinadas a la financiación de la justicia gratuita que tiene que ir por un lado y las destinadas en todo caso a compensaciones o a coberturas de este tipo como las de los fallidos que son conceptualmente una cosa distinta y la normativa jurídico financiera del gobierno

señor erkoreka yo no tengo ninguna duda que nada tiene que ver

el que este grupo haya presentado la interpelación y que usted tuviese aquí que comparecer

por parte del colegio de abogados de bizkaia que por cierto iban a ser

nada tiene que ver no es cuestión de que este grupo quiera ponerse una medalla yo lo atribuyo

y el tiempo oportuno sino a una casualidad aunque de medallas usted que pertenecía en el grupo en el congreso esta parlamentaria en foros distintos al de esta cámara ha asistido a que teniendo

de diputados de trescientos cincuenta pues han intentado ponerse medallas de aprobación

nacionalista pero en fin ya le digo nada tiene que ver y estoy seguro que nada tiene que ver ni nuestra iniciativa

medidas de presión del colegio de abogados porque le digo los colegios confiaban mucho en este nuevo gobierno precisamente porque aunque es cierto que usted aquí viene a hablar del gobierno y no en nombre del partido nacionalista vasco como ha dicho

consejero sí que es cierto que como el partido nacionalista vasco había mantenido la misma opinión que los colegios profesionales y que este grupo en esta cámara

el que fuera a llevar a partir de ahora el tema de la justicia

le dieron un margen de confianza y medidas de presión que tenían determinadas de antes

como la huelga en enero las desconvocaron y no presentaron

y por eso este grupo a pesar de que presentó el decreto que nosotros no vemos esa dificultad extrema que usted le ve y es más le digo señor erkoreka ahora ya claro que ha quedado desfasado pero si se hubiera derogado el decreto nada más que usted llegó al gobierno créame

porque también los plazos se pueden acortar verdad y muchas de las conversaciones y de las consultas que se tienen que hacer estaban ya hechas pero en fin dada la dificultar extrema a eso este grupo confió y simplemente

la exigencia que le hacía a su departamento transformándola en que se resolviesen las disfunciones porque era de lo que se trataba que el acceso a la justicia gratuita fuera más fácil que lo es con el actual decreto y yo le he planteado distintas cuestiones

muchas cuestiones le he planteado que en este momento el servicio de orientación jurídica

está como está y desde luego yo no sé si ustedes han estado en contacto en todo momento

que le dé a las conversaciones y a los acuerdos un sentido distinto y diferente del que le daba el anterior gobierno

que entendía por conversaciones y acuerdos cosas

pero yo no sé si hubo o no hubo el caso es que los letrados

iban a ser secundados por álava y por gipuzkoa formalizaron finalmente la demanda contra el decreto el dieciocho de febrero ante la sala de lo contencioso del tribunal superior de justicia el servicio de orientación jurídica fue cerrado el veinte de febrero y para hoy con inicio de fecha de hoy estaba lo que

de turnos de oficio ya le digo in extremis como sea ha llegado

un acuerdo y eso desde luego es lo que nosotros le solicitamos que este

señor erkoreka para que llegue a un acuerdo con ellos para que las disfunciones se solucionen y sobre todo para que como va haber que hacer un nuevo decreto y no me interpele a mí yo no soy el gobierno yo comprendo que usted echa de menos el congreso de los diputados

y no sé lo que va a pasar con el borrador si va a contener aportaciones si el anteproyecto

eskerrik asko legebiltzarburu andrea no le interpelo a usted señora llanos

con una gran de capacidad de influencia y de condicionamiento de lo que hacemos los demás está llevando a cabo que entran en abierta contradicción solo eso no y luego

partido para que me pasara información privilegiada para que gracias a su mediación pudiera enterarme unos días antes de que de repente

que un viernes determinado aprueba el gobierno cambiando radicalmente las condiciones de la justicia gratuita cuando el miércoles estuvimos debatiendo aquí en comisión usted y yo sobre ese mismo tema quería servirme de su influencia en madrid para que me pasara esa información

derogar el decreto anterior y reestablecer limpiamente sin ninguna otra consideración el que estuvo vigente con anterioridad no sé si los trámites internos del gobierno que son importantes en lo que se refiere a la actividad normativa hubiesen permitido que en tan poco tiempo la norma pudiera estar en vigor

lo que sí le puedo decir es que muy probablemente

servicios jurídicos del gobierno nos hubiesen dicho si lo que pretenden con esta operación es que en el futuro

se financien en el marco del decreto tirando del mismo fondo presupuestario no porque esto ya se lo hemos dicho en otras ocasiones que no

informe o con varios informes negativos

cómo se le ocurre aprobar un decreto que va en contra de los informes jurídicos del gobierno porque en ese terreno hay una doctrina

económico normativo yo esto es lo que quería explicarle a usted cuando la semana pasada le ofrecí esa conversación quería explicarle detalladamente cuál era mi plan y cuál es el marco el que tiene que moverse cuáles son las limitaciones en las que necesariamente tiene que desarrollarse pero como usted

la interpelación tenemos que debatir aquí públicamente y no es este el foro idóneo para que cite yo los informes internos del gobierno que no están por la labor

lo más probable si son coherentes y lo serían con los pronunciamientos que

claro si usted con esta operación pretende restablecer los pagos incondicionales que el pasado se establecían para la justicia gratuita esto

que me ha planteado muchas cuestiones sí me ha planteado muchas cuestiones y todas ellas están siendo objeto de estudio de tratamiento conjunto con los

y yo no le voy a dar ahora un cronograma de las relaciones que vamos a mantener con ellos porque no soy capaz de hacerlo sería imposible que lo hiciera porque entre otras cosas ese

tiene que ser fruto del encuentro con ellos y del consenso con ellos lo que sí le puedo decir es que el planteamiento del departamento que dirijo es leal

es serio quiere afrontar este problema de la manera más coherente y más satisfactoria posible para todos en beneficio de la justicia gratuita en beneficio de la tutela judicial efectiva a pesar de los inconvenientes que resultan del hecho de que tenemos en ciernes una reforma legal que

seguramente el marco en el que nos tenemos que mover y que ese horizonte no puede ser

a la hora de reformar el decreto y a pesar de encontrarnos insisto con sorpresas como la del real decreto ley del viernes anterior que hacen que mire la semana pasada cuando usted y yo debatíamos sobre este particular el miércoles

era ilegal o no ahora ya sabemos que es ilegal pero en fin nos lo hemos encontrado de bruces en el boletín oficial

por tanto estas dificultades intentaremos solventarlas de la mejor manera posible y si eso requiere una modificación del decreto en tiempo suficiente antes de que se apruebe la ley

el marco de la justicia gratuita para todas las comunidades autónomas y para todos los que tienen competencias en este ámbito pues abordaremos formalmente la reforma del decreto pero insisto yo estaré dispuesto a informarle cumplidamente a usted de lo que son los propósitos del gobierno aquí en este formato de interpelación desde la tribuna

señor consejero en reciente sesión plenaria se aprobó una enmienda de transacción en relación con la situación que al parecer afecta a los

al parecer porque a lo largo de aquel debate surgieron incluso dudas de si

que había trabajado para la administración pública estaba o no dentro de estas personas el acuerdo recoge

el siguiente texto cualquier decisión relacionada con la retribución extraordinaria del mes de diciembre de dos mil doce de los trabajadores interinos del sector público vasco

en su sentencia lo que supone trasladar la decisión de su devolución hasta el pronunciamiento del tribunal constitucional claramente lo que le está pidiendo este mandato parlamentario es que incumpla la ley una irresponsabilidad desde nuestro punto de vista de los grupos que firmaron ese acuerdo pero uno de esos grupos que lo firmó es el grupo parlamentario que sustenta a este gobierno por tanto señor consejero lo que queríamos preguntarle y lo dijimos

la intención de su departamento si va a dar cumplimiento o no al mandato parlamentario en relación con los contratos finiquitados a personal eventual del sector público vasco muchas gracias

señora quiroga la respuesta a su pregunta tiene que ser necesariamente positiva me pregunta

lo que a mi atañe como consejero del gobierno aunque no todos los contenidos de la resolución me son directamente exigibles a mí en lo que a mi atañe le puedo asegurar que me esmeraré haré todo lo que esté al alcance

y leal a esa resolución a los cuatro puntos usted en su intervención cuando se debatió aquel tema hizo referencia básicamente al cuarto ahora veo que se refiere básicamente al tercero pero hay otros dos también y mi intención insisto como miembro del gobierno que soy

de la resolución no puede ser de otra manera gracias eskerrik asko

gracias señora presidenta señor consejero si le preguntamos esto es porque usted es consciente y porque supongo que será consciente que lo que le están pidiendo con ese mandato parlamentario es que incumpla le ley es decir que

que no se sabe por qué yo no le hago responsable a usted porque no ha sido usted el responsable de esta situación eso es evidente y ha sido el gobierno anterior pero usted ha heredado esa situación entre otras

de yo creo que en esos momentos de una huida hacia adelante del gobierno del señor lópez con respecto a una decisión complicada de un momento complicado que a nadie nos gusta que se hubiera tenido que tomar pero esto es un agravio comparativo en relación a otros funcionarios de la administración a los que se les ha eliminado

hasta que el tribunal constitucional se pronuncie

qué hacemos si la pedimos o no la pedimos esto es lo que esta ocurriendo

con estas personas que han estado trabajando de forma eventual para la administración pública y a las que

en esta situación también consolidando una situación de inseguridad jurídica porque fían a la sentencia del tribunal constitucional la devolución o no o la satisfacción de esa cantidad lo que le está pidiendo este mandato parlamentario es que cometan una ilegalidad

durante no sabemos cuánto tiempo en principio cinco meses pero no lo tenemos claro lo que le queremos preguntar desde el partido popular y usted lo entiende perfectamente es si este gobierno aún cuando es un mandato parlamentario va a mantener una situación de ilegalidad porque usted además como responsable del departamento de justicia no está dando buen ejemplo por tanto queremos saber

está sustentado con el grupo que mantiene este gobierno va a mantener una situación de ilegalidad eso es lo que queremos saber además de la cuestión de si realmente existen o no casos porque aquí se llegó a negar que existieran casos de personas que han recibido

empezando por el final no me consta a mí personalmente que existan casos

esas cantidades no me consta no sé si usted me puede dar algún dato más aquí hay gente a la que le gusta

confundiendo lo que yo digo con lo que se me atribuye pero por lo menos

concréteme a que caso se refiere me gustaría tener señora quiroga la claridad que tiene usted para la exégesis del ordenamiento jurídico y poder ver lo que significa una

con la claridad y nitidez con la que lo hace usted porque claro a partir del momento en el que un auto del tribunal constitucional suspende la aplicación de un acto de fecha desconocida que supone una determinada interpretación de la ley que prohíbe

situación que desde un punto de vista jurídico es cuando menos dudosa cuando menos dudosa porque no se está hablando del fondo del asunto se está hablando de si hasta que no se resuelva ese pleito

las administraciones en este caso la administración vasca pagó en concepto de retribuciones de finiquito de lo que fuera a los empleados públicos que formaron parte de sus plantillas durante ese periodo en concepto de paga extra la parte proporcional correspondiente tiene que estar en las cajas de la administración o tiene que estar en los bolsillos de quienes los percibieron

provisional una decisión provisional que determina si durante ese periodo hasta que se produzca el pronunciamiento del tribunal constitucional sobre el fondo del asunto dónde tiene que estar ese dinero

o en la caja de la administración esa es la cuestión yo esto no lo veo claro por eso pedimos un informe jurídico

y eh bildu lo pidió y lo tienen y ese informe jurídico a mi juicio sólido y consistente es el que sirve de base para no veo dónde está el problema cuando el gobierno dice o asume

próximamente un pronunciamiento en relación con el incidente de suspensión tiene que pronunciarse sobre el

por lo menos va a tener dos ocasiones para emitir un juicio al respecto en una cuestión que a mi juicio por lo menos es dudosa y lo es también para los servicios jurídicos del gobierno a los que les encomendé el análisis de la cuestión el informe si quiere se lo remito también a usted otros grupos
lo han recabado ya muchas gracias eskerrik asko

o mejor dicho el gobierno vasco está atendiendo a miles de personas a miles de familias

de otros recursos económicos o por ser estos insuficientes necesitan esa renta de garantía de ingresos y necesitan también la prestación complementaria de vivienda para mantener unas condiciones de vida mínimas no sé si dignas pero mínimas

redujo esta cantidad pero también resulta ser cierto que cada año son más las personas y las familias que recurren a estas ayudas

mínimas gracias a ellas el número de personas y de familias que estando en riesgo de pobreza pueden mantener esas condiciones de vida

ha aumentado de forma estable y de forma notable en los últimos años

relevante cada vez llegamos a más personas a personas que necesitan esta ayuda y como les decía

cada vez la rgi funciona como un auténtico

en este país no creo que haya en este parlamento nadie que no quisiera elevar esas prestaciones

y socialmente sostenible los recursos de la administración son los que son yo el otro día le trasladaba

que yo sinceramente no sé cómo se hace eso

el empleo también se reduce el nivel de ingresos públicos como consecuencia esa es la realidad más demandantes y menos recursos

euskadi junto con nafarroa es con mucha diferencia la comunidad autónoma con mayor grado de cobertura en esta materia

que muchas de las otras comunidades no llegan casi a los cuatrocientos euros en euskadi es de seiscientos dieciséis como usted decía más los doscientos cincuenta

es un elemento más junto con las ayudas de emergencia social el esfuerzo solidario

es importante muy importante pero a veces manda más la demagogia hablar del fraude social del fraude fiscal de los tipos del irpf lo cierto es que la única manera de aumentar los recursos destinados a las políticas sociales es mediante un mayor esfuerzo colectivo y solidario

egiten ari gara orain azalduko dudanez tal y como explicamos en la comparecencia del día seis de febrero

dentro de los objetivos generales que presentábamos en esta legislatura en materia de vivienda queríamos orientar nuestra política hacía la atención de las situaciones de necesidad social derivadas sobre todo de la crisis económico

en la medida de lo posible entre esas necesidades sociales se incluye la atención a las situaciones de desahucio que dejan a personas y familias sin un techo en el que vivir

ni tampoco todos los desahucios son iguales afortunadamente en los últimos meses estamos asistiendo a numerosas iniciativas

hay una entidad financiera que ha admitido la dación en pago y también de otras instancias o instituciones públicas se están dando pasos para evitar que las personas

a una hipoteca actualmente el parque de viviendas

tal y como dijimos en la comisión ofrece alojamiento de forma prioritaria y urgente a determinados colectivos por eso décimos de las palabras a los hechos colectivos como son las personas víctimas de maltrato por ejemplo entendemos como ya lo hizo por cierto el ejecutivo anterior que tanto el decreto treinta y nueve barra dos mil ocho de cuatro de marzo sobre el régimen jurídico de las viviendas de protección pública como la orden de cuatro de noviembre de dos mil nueve sobre las condiciones de cesión y el procedimiento de adjudicación de vivienda

legal para incluir en esos supuestos a las personas que han sufrido un desahucio por eso decíamos que no procedimiento general sino procedimiento específico desde que hemos asumido la responsabilidad de gestión dos meses son ocho las adjudicaciones que ya hemos realizado

las que actualmente están en trámite de personas que son desahuciadas y que les ofrecemos una vivienda y además hemos evitado treinta y uno desahucios
en el propio parque de viviendas de alokabide eskerrik asko

y en relación con la comparecencia del día seis a la que se ha remitido en varias ocasiones en esta mañana tenemos que decir que el documento que se nos entregó a los grupos políticos tras sus explicaciones

planteaba como objetivos a corto plazo el primero de ellos iniciar e intensificar las negociaciones orientadas a constituir una mesa fuerte de diálogo social

el primero de ellos era la consolidación del diálogo social por tanto le pregunto

cuándo tiene previsto el gobierno constituir la mesa de diálogo social

bai mahaiburu andrea si no recuerdo del todo mal creo que ya respondí por escrito

hace aproximadamente un mes la pregunta fue es intención del gobierno mantener la mesa de diálogo social y la respuesta fue que sí

y fue que sí porque creemos en el diálogo social la pregunta de hoy avanza un poco más cuándo tiene el gobierno vasco prevista la constitución de la mesa de diálogo social la respuesta a mi modo de ver es también sencilla

después de cumplir ese objetivo a corto plazo de iniciar las negociaciones cuando se den las condiciones mínimas que posibiliten la adopción de acuerdos en los temas más relevantes que afectan al conjunto de trabajadores y trabajadoras

de hacer escenificaciones de negociación sin contenido ni perspectivas de acuerdo alguno eskerrik asko aburto jauna

la sociedad está viviendo un drama colectivo de proporciones casi apocalípticas y de eso yo creo que todos tenemos conciencia aquí por lo menos en la calle nadie es ajeno a ese sentimiento

esto no es una cuestión presupuestaria es una cuestión de voluntad política de voluntad política sí aunque no hubiera sido malo que antes de preparar el proyecto de presupuestos hubiera habido ya un encuentro en esa mesa de diálogo social hacerlo después eso sí que no es garantía de éxito porque ante unos presupuestos comprometidos difícil será encontrar acuerdos a posteriori ustedes no pueden abdicar de liderazgo que les corresponde como gobierno y mucho menos subordinarlo

porque la espera sine die de alguno de los llamados a esa mesa

es un impedimento para la constitución de la misma y ni siquiera la presencia de todos los miembros llamados garantiza

pero es preciso poner en marcha ese mecanismo su obligación es gobernar porque esperar la disponibilidad de todos los llamados es permanecer en una actitud pasiva y por lo tanto esa actitud no se corresponde ni con los tiempos que vivimos y mucho menos con los expeditivos discursos que el grupo nacionalista cuando estaba en la oposición usted sigue sin dar fechas probablemente porque tiene el temor a que no surjan los acuerdos

son tiempos para gobernar con decisión y desde luego gobernar sin miedo usted nuevamente no concreta hoy como no concretó en la comisión y entonces usted mostró su mal sabor de boca se mostró ofendido porque le hicimos saber que efectivamente faltaba concreción si quiere hoy puede demostrar igualmente esa sensación

o de sentirse ofendido pero no será más que un ejercicio de hipocresía si no es capaz de darnos aquí unas fechas o un horizonte temporal el grupo socialista le plantea que esa mesa tendría que reunirse antes de la presentación del proyecto de presupuestos o en su defecto teniendo en cuenta que en el próximo mes de julio con el fin de la ultraactividad cuatrocientos mil trabajadores vascos van a perder su convenio por esa razón se hace urgente convocarla

es verdad que hay una contestación por escrito sí pero también está en el diario de sesiones que usted dijo que la convocaría aunque no estuvieran todos y eso está

por lo tanto insisto usted también dijo que entendía que el convenio sectorial era preeminente sobre los convenios de empresa aunque no fueran incompatibles
y precisamente por esa razón se hace urgente convocar esa mesa eskerrik asko itxaso jauna amaitzeko jaurlaritzaren ordezkariak aburto jaunak dauka hitza

muchas cosas incluso parece que me comprometí a una serie de cosas que usted hoy tiene la oportunidad aquí de reclamar mire yo lo que no voy a hacer es insultarle no vamos a subordinar en ningún caso el diálogo a ninguna estrategia de nadie se lo vamos a demostrar

y no tenemos ninguna actitud pasiva sabemos y no lo hemos negado en ningún momento

en la que nos enfrentamos por muchas razones las ha apuntado usted la crisis las dificultades de las empresas las dificultades de los y de las trabajadoras

para la negociación nos han cambiado las reglas en mitad del partido cambios en la legislación laboral estrategias divergentes en el mundo sindical no obstante se lo dije por escrito y se lo repetí en la comisión

y creemos en el diálogo social porque puede ayudarnos a salir de la grave situación actual creemos en el diálogo social porque el acuerdo creemos que es la base de una convivencia ciudadana la perspectiva que se nos presenta no es buena cierto

no estamos quietos no estamos pasivos dos y hasta tres reuniones en estos momentos con las cúpulas de cada uno de los sindicatos

por eso entendemos o mantenemos abiertas todas las vías de diálogo y por eso

para convocar la mesa de dialogo social cuando haya una posibilidad de diálogo fuerte como dije en la comisión y posibilidad también de acuerdo no somos unos ilusos ni unos irresponsables y menos

creemos que el diálogo social que incluya a todos los agentes es más fructífero lo creemos así sabemos que algunos han decidido no estar lo están demostrando día a día

nosotros a pesar de eso lo vamos a seguir intentando porque uno no puede prescindir de los principios en los que cree profundamente no obstante yo le garantizo el partido se va a jugar y se va a jugar con aquellos que quieran porque creemos en el diálogo social y por cierto

no es tan bucólica como usted describe en la presentación de su pregunta eskerrik asko aburto jauna gai zerrendako hemeretzigarren puntua galdera

me solicita criterio el criterio para qué para iniciar conversaciones para seguir adelante para qué los criterios son herramientas para tomar decisiones

cuando manifestamos nuestro interés y cito en analizar y estudiar la viabilidad y la oportunidad del proyecto

estamos diciendo que no tenemos una posición predefinida sobre dicho proyecto por lo tanto ni lo desechamos ni lo apoyamos

que el gobierno no tiene una postura prefijada sobre el mismo si la tuviéramos la comunicaríamos y la defenderíamos aquí ante el parlamento y la sociedad eskerrik asko

gracias señora presidenta señora consejera

usted no contesta a las pregunta que le hago nunca ni en la comparecencia ni por escrito ni aquí la última por escrito a una pregunta fundamentada

respecto a este asunto sí son compatibles sin razones y yo sé que usted está preparada para argumentar otra cosa es que tenga razones a la siguiente qué planteamiento concreto mantiene en relación a este proyecto ezer ere ez

y es que no nace este asunto hoy aunque usted nazca en este gobierno para este asunto políticamente no nace

hay multitud de datos en la hemeroteca de posición política del partido nacionalista vasco y usted no tiene criterio claro que se lo pido es que tiene que tenerlo

para decir que sí o que no o después de dos meses todavía no ha analizado esto se lo pregunté en la comparecencia dos veces

mire nos preocupa porque han anunciado que el recorte en cultura superará el veinte por ciento y sin embargo ha respondido que retomará las conversaciones y da la impresión por su respuesta que después de un

un proyecto faraónico que ha sido contestado en la comarca en bizkaia y políticamente rechazado

que han costado mucho dinero resulta que el lehendakari no encuentra dinero para ayudar a las pymes

y usted va a analizar si gasta ciento treinta y tres millónes solo que está analizado costaba el edificio cuatro coma tres millónes al año de mantenimiento tiene algún criterio de partida de estrategia museística de política cultural algo que le permita argumentar

como está ocurriendo con este gobierno habitualmente que van a analizar porque no ha dado una sola razón

y de otra manera para que discutamos con más amplitud

la renovación del acuerdo con la fundación solomon

en su respuesta en la que me dio por escrito y eso sí es una irresponsabilidad porque habla usted de ampliar la relación sabrá lo que escribe lo que firma

y ampliar la relación significa porque sabrá que hay que renovar ahora

que tiene unas condiciones leoninas para las administraciones vascas que hay unas orientaciones para tomar

si por lo menos va a tener usted en cuenta esas orientaciones en esa renovación y por favor sea responsable y no introduzca que simplemente discutirlo

el asunto del guggenheim urdaibai en la renovación de ese acuerdo porque va a hundir

la capacidad de decisión de euskadi en el guggenheim de bilbao y de eliminar el carácter de franquicia que de hecho ahora tiene lo que ocurre

un criterio o no pero responde al dictado de los intereses

del partido que sustenta a este gobierno y orientados además por el señor bilbao el diputado de bizkaia y eso es evidente en sus silencios y en sus no respuestas y lo iremos viendo con el tiempo

señor reyes como le he dicho no tenemos una postura prefijada

o más aún cuando haya intención de empezar a analizar el asunto en profundidad me repito lo sabrán inmediatamente eso significará que cuando llegue ese momento

un análisis de mercado un estudio del impacto económico una definición de proyecto un estudio de viabilidad y una reflexión que nos va a llevar a tomar una decisión

aztertu eta baloratu beharko dugu aurkezten den proiektua bere osotasunean en cuanto a su valor estratégico sepa señor reyes que no vinculamos su posible construcción a la renovación del convenio con la fundación solomon guggenheim

la renovación no depende de la aprobación o no del proyecto lo que he manifestado en anteriores ocasiones es que para nosotros la propuesta de guggenheim

tiene sentido si se entiende como una profundización de la relación entre euskadi

reforzando su influencia y su impacto euskadi debe seguir apostando por la innovación y la renovación por nuevas maneras de poner en valor la cultura el arte y la naturaleza no sabemos si se hará y sabemos menos aún cuándo y cómo se haría

evidentemente la situación económica actual no permite embarcarse ahora mismo en la construcción de nuevas infraestructuras hecho que no implica no reflexionar más a futuro más adelante en un futuro errepikatzen dizut momentua heltzen denean

no se preocupe también reflexionaremos sobre la mejor manera de comunicar nuestras propuestas y de compartirlas y discutirlas con toda la sociedad eskerrik asko eskerrik asko

unas económicas para reclamar el repliegue de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en euskadi nos ha dicho que la policía nacional y la guardia civil nos cuesta

un gasto que considera excesivo en tiempos de crisis es difícil de entrada precisar el coste económico que requiere la seguridad de las personas en un país

como se ha hecho en euskadi durante tantos años pero creo que los argumentos económicos en materia tan delicada son bastante imprudentes y se pueden volver contra usted y contra su departamento porque por la misma regla de tres habrá quienes se pregunten en esta misma cámara si no es excesivo lo que la ertzaintza cuesta por ejemplo quienes culparon a nuestra policía y no a quienes tiraban petardos y bengalas en los recientes

pero además no entendemos bien qué quiere decirnos cuando nos habla

nos está sugiriendo que con el repliegue de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que propone las haciendas vascas

que podrían dedicarse a gastar en más en lucha contra la crisis mejoramiento de los servicios públicos y reforzamiento

por eso señora consejera le pregunto en nombre de mi grupo cuál es la valoración del coste económico para las haciendas vascas

andrea bien señor unzalu la administración del estado tiene en euskadi catorce mil doscientos sesenta y uno funcionarios el cuarenta y cinco por ciento son fuerzas y cuerpos

para las fuerzas armadas según los datos facilitados por la administración central en marzo del dos mil doce en respuesta a una pregunta parlamentaria en el congreso de diputados en enero de dos mil doce había tres mil sesenta guardias civiles y mil quinientos veinte policías nacionales es decir

efectivos destinados como usted sabe a cubrir servicios policiales de carácter extracomunitario

incluyendo en dichos conceptos lo relacionado con la lucha antiterrorista pues bien una simple regla de tres comparativa con el coste de los efectivos de la

esta sociedad está soportando una situación de dimensionamiento y sobrecoste innecesarios incompatibles

socioeconómica actual muchas gracias eskerrik asko beltrán de heredia andrea

sailburu andrea pero sinceramente usted no me ha respondido a lo que yo le he preguntado usted ha hecho una respuesta además escasamente convincente

entiendo que usted hizo unas declaraciones desde mi punto de vista demagógicas y esto siempre suele ser difícil de defender usted que aún no ha aclarado qué políticas quiere desarrollar qué quiere hacer con la ertzaintza

sus planes y su modelo de seguridad ya ha dicho lo que tiene claro desde el primer momento

no sabe aún lo que va a hacer al frente de su departamento pero sí sabe

lo sabe entiendo yo por motivos ideológicos y no por datos concretos que en este momento tampoco ha sido no nos aportado

y sabe además que reclamar el repliegue de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado es un recurso fácil propagandístico

y recurrente incluso que a usted le ha servido para ocultar sus propias carencias en principios de seguridad y reconozco que en su comparecencia ante la comisión

no hablar de lo que iba a pasar con la ertzaintza con nuestra policía

al día siguiente eso es lo que los medios de comunicación reflejaron mayoritariamente nosotros no vamos a hacer caballo de batalla de los ajustes que haya que hacer en euskadi en el número de agentes de policía nacional y guardia civil para el cumplimiento de sus funciones específicas es una cuestión técnica que tiene que ser determinada por la junta de seguridad y que para eso está la junta de seguridad para hablar de estas cuestiones técnicas pero señora consejera no convierta usted esto en una cuestión de combate ideológico

que deja mucho que desear señora consejera deje usted de hacer demagogia

repito lo que ya le he expresado en mi primera intervención y me ratifico en las valoraciones que han motivado su pregunta

soporta una situación de sobredimensionamiento y en consecuencia de sobrecoste innecesario e injustificado en materia de servicios policiales de seguridad los datos son elocuentes al cierre del ejercicio presupuestario de dos mil doce el programa

a sus servicios de seguridad y digo ejercicio dos mil doce por tanto tiene que conocer usted perfectamente estas cifras el coste

ertzaintza en servicio supuso seiscientos dieciséis millónes de euros para un colectivo de ocho mil agentes este es el coste directo para las haciendas

materia de seguridad directa del departamento de seguridad

correspondiente a las funciones y servicios policiales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado

gastos asumidos por el estado para aquellos conceptos de seguridad y servicios policiales residuales que han quedado de esta manera de acuerdo a lo que desarrolla el propio estatuto

que si extrapolamos los datos de la ertzaintza y aplicamos una simple regla de tres el conjunto

que están actuando en euskadi estamos hablando de un presupuesto muy superior a los trescientos cincuenta millónes de euros anuales

los datos concretos y contrastables por parte de la administración estatal algo que a todas luces

y sobre todo es excesivo en comparación a las competencias policiales

tal y como esta definida como policía integral titular de la generalidad de las funciones policiales estamos hablando de que disponemos de más de quinientos policías por cada cien mil habitantes y esto sin contabilizar

porcentajes que nos alejan mucho de los ratios que operan en los países más avanzados y sobre todo nos alejan de la media europea llevamos ya un año y cuatro meses sin la excepcionalidad de la amenaza terrorista directa de eta

ante la evidencia de los datos y la responsabilidad de una gestión eficiente algo que efectivamente hay que discutir en la junta de seguridad y para eso hemos solicitado su

buruz garrido andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea sailburuok a medida que avanza este comienzo de legislatura

como las verdaderas intenciones de este nuevo gobierno bien es cierto que las declaraciones efectuadas concretamente en el ámbito sanitario están generando dudas

pendientes y su posible paralización se nos ha dicho por activa y por pasiva y especialmente por el máximo responsable de este gobierno

el señor gatzagaetxebarria consejero de hacienda y finazas en la comparecencia en el parlamento vasco no fue tan tajante

en sanidad o educación el consejero de salud el pasado dieciocho de febrero en la comisión correspondiente

es decir dejo muchas dudas y un horizonte de incertidumbre en relación a infraestructuras sanitarias en marcha en ejecución como usted bien sabe señor consejero el el hospital de eibar el hospital universitario de álava

de finalizar su ejecución como digo muchas de ellas infraestructuras básicas para mantener una sanidad de calidad en el futuro días después

conocimos que los ajustes serían por un importe de ciento ochenta millónes de euros aproximadamente un cinco por ciento del presupuesto a través de otras declaraciones también fuera del parlamento vasco realizó la siguiente afirmación se debe preservar en lo esencial

en relación a las infraestructuras sanitarias previstas por eso le hemos preguntado qué criterios se han seguido para considerar que ahorrar en lo accesorio puede implicar paralizar infraestructuras

ahorra en lo accesorio puede implicar paralizar infraestructuras e inversiones previstas discúlpeme

entiendo que no es tuvo presente en la inauguración del congreso de hospitales al que me hace referencia

nosotros en ningún momento hemos asociado estas dos ideas de forma directa como usted afirma todas las veces que he señalado que vamos a preservar lo esencial

es me voy a ratificar en que en esta legislatura

público y de calidad y velar

me ha hecho referencia también a lo que dijimos durante la presentación de las líneas generales del departamento bien

han quedado más obras previstas en osakidetza que las que probablemente

del departamento de salud por otra parte también se lo digo

se van a poder priorizar sin que esto constituya ninguna tragedia sanitaria como verá

las infraestructuras pendientes y las que estimemos que tenemos que hacer de acuerdo al presupuesto y nada ratificarme una vez más como ha reiterado varias veces el lehendakari

y vuelvo a repetir una infraestructura poco adecuada

dará un servicio excelente y lo contrario un mal servicio eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna

la invitación correspondiente para estar en el mismo señor consejero igual es porque usted es nuevo en esta nueva responsabilidad pero sí sería conveniente que en cuestiones que se puedan ser interesantes en un futuro

del parlamento vasco pero sí me ciño a lo que me han podido trasladar personas que han estado en ese congreso y también a sus declaraciones que fueron recogidas por numerosas agencias y medios de comunicación

lo que dijo que había que ahorrar en lo accesorio para

lo esencial y usted en la comisión dijo claramente que había algunas infraestructuras que se

en un medio de comunicación no en el parlamento vasco porque en la comisión del dieciocho de febrero cuando fue preguntado de forma

usted se despachó diciendo que no tenían un presupuesto de inversiones cerrado pero es que días después en un medio de comunicación usted ya le dio la cifra entonces o hizo las cosas muy rápido o le puso el señor urkullu unos deberes que los tuvo que hacer con mucha celeridad pero en la comisión correspondiente en el parlamento vasco usted no señaló cuál era el presupuesto cerrado que días después lo dio

ochenta millónes de euros de recorte y dijo precisamente además que algunas infraestructuras no se iban a realizar

y está recogido en una entrevista que no ha sido desmentida que este año desde luego no va en los presupuestos

a sus declaraciones como digo que no han sido desmentidas a día de hoy y lo que queremos es claridad

si para este gobierno ahorrar en lo accesorio es paralizar inversiones sanitarias previstas y preservar lo esencial por ejemplo es mantener una administración pública absolutamente dimensionada financiar por ejemplo ikastolas en francia

este gobierno nos diga dónde están las prioridades queremos claridad eskerrik asko garrido andrea

garrido andrea discúlpeme el departamento de salud no ha organizado ningún congreso yo no soy quien para invitarle tomo nota

y consumo pueden ver tomo nota que tenga por seguro que será invitada me vuelvo a reiterar no creo que estaba previsto este año

más que el edificio de consultas externas y el plan no creo que había más

en cualquier caso me vuelvo a reiterar nosotros vamos a mantener el servicio sanitario como de calidad como usted va a comprobar a lo largo de la legislatura en el resto como siempre en función del presupuesto iremos priorizando las cosas osakidetza lleva mucho tiempo con bastante inversión tenemos unas buenas infraestructuras

yo le agradezco que ponga en conocimiento de toda la cámara que la edición de este pequeño libro

le agradezco también de igual manera que nos diga que el coste que para las arcas públicas supone son dos mil cuatrocientos noventa y siete euros que son los gastos de distribución

la respuesta dada por escrito ni ahora es en qué medida casa esto con la

en la que vino a señalar las líneas maestras de su departamento que tenía que ver con la buena gobernanza a usted le parece mas allá de que

editar menos soporte en papel y por tanto devastar menos árboles le parece que este libro es en concreto un buen ejemplo del modelo de buena gobernanza

porque esto le puede parecer desmesurado para con la pregunta relativa a este libro pero tiene una relación directa que intentaré explicarle

en la gestión de lo público y que tiene que ver con la independencia de lo público y con la primacía de lo público en el gasto de lo público frente a los intereses privados

y marcado también por las puertas giratorias puertas giratorias que permiten instalar en consejos de administración a políticos que durante su tiempo en la acción política en la acción y gestión de lo público

sus enriquecidos huesos es curioso además que se siga promocionando a empresas que lo que hacen es obra tras obra pública generar sobrecostes que nos tragamos que nos comemos la sociedad

han financiado este libro son empresas que también se han caracterizado por acometer obra pública con sobrecoste que hemos pagado como si no fuera importante

y sé que esta pregunta puede parecer fuerte pero es que la respuesta está en este hermoso libro

son empresas que están vinculadas a unos papeles que no son apócrifos porque son los papeles del señor bárcenas

que contraprestaciones como estas no tengan que ver también con un pago de favores que tiene que ver con su papel predominante en la gestión del dinero de todos y de todas para que luego de una manera bastante delictiva vaya a lucrar las arcas de algún particular eso es lo que nos preocupa fundamentalmente y eso es lo que no vemos en esta buena gobernanza hay quien dice en tiempos como estos que
con los políticos y políticas soporta una pesada losa a partir de hoy también una pesada prosa eskerrik asko

señor matute a mí me pueden preocupar las mismas cosas que le preocupan a usted en ese sentido

la opinión de nuestro departamento es que tenemos que ser cuidadosos y cautelosos con los recursos públicos

poner a la disposición la información que tenemos en el departamento sobre todas las cuestiones que llevamos adelante obras etcétera creo que es un buen ejercicio de transparencia pero evidentemente no comparto el que tenga que ser con ese tipo de pesadas prosas como ha dicho usted al final hay otras maneras también de dar a conocer los proyectos y además creo que cuando

con determinados tipos de ediciones debe de ser medido

cuando estamos pensando en publicaciones que quieren perdurar en el tiempo un proyecto tiene una vigencia de un momento

puede perfectamente explicarse de otras maneras y no necesariamente con toda esa publicación en todo el resto de consideraciones